beti ere akordio borondatearekin he mantenido en todo momento una posición de prudencia y respeto en relación con la vía y las decisiones que han ido adoptando la sociedad y las instituciones catalanas he defendido el diálogo y la negociación política

encontrar una solución he apuntado al modelo escocés al modelo del reino unido como un referente para conjugar el principio de legalidad con el principio democrático tras los acontecimientos de estos últimos días

ha desbordado algunos límites que requieren un pronunciamiento expreso uno un conflicto político con alto arraigo social

ni la imposición ni la vía judicial y mucho menos la vía penal son la solución dos el conflicto sobre cataluña

a un marco de diálogo político e institucional es necesario llevarlo del callejón sin salida a la mesa de diálogo tres

el reto fundamental desde el punto de vista de la responsabilidad política es

ya sea interna o entre diferentes ámbitos territoriales o institucionales desde el punto de vista democrático la responsabilidad es articular mecanismos consensuados para que las sociedades y los pueblos puedan expresar su voluntad sobre su futuro cuatro el punto de partida es el reconocimiento de la existencia de un conflicto entre voluntades sociales mayoritarias que

se manifiestan de formas divergentes en cataluña en euskadi y en el resto del estado español cinco propongo promover un proceso de diálogo político e institucional que permita conciliar democráticamente las aspiraciones mayoritarias de las sociedades

la voluntad de diálogo se demuestra con gestos muy sencillos tan sencillos como abrir la puerta al diálogo con voluntad de entendimiento y acuerdo

queremos sumar colaborar para que euskadi siga creciendo cuente con mayores capacidades y recursos sea más abierta y reconocida en el mundo

la sociedad adquiera un mayor protagonismo e implicación crecer construir una acción desde el respeto la responsabilidad y el pacto

sobre esta base planteo mi intervención presento los cuatro pilares que estructuran el programa de gobierno desarrollo humano integración social empleo y reactivación económica convivencia y derechos humanos

son nuestros pilares en un contexto de profundas transformaciones hemos transitado por una grave crisis económica que ha afectado al bienestar de la ciudadanía y la cohesión social

que afecta a todas las esferas de las políticas públicas no podemos desdeñar todo lo creado y construido hasta el momento tampoco instalarnos en una acomodación acrítica

es cierto que el crecimiento no está acompañado por la creación de empleo de calidad en la medida que desearíamos

de salud y protección social es cierto que el avance logrado en la equidad en la educación tiene que venir acompañado por una decidida apuesta por la excelencia es cierto que la internacionalización de euskadi va a requerir un mayor esfuerzo compartido por todas las instituciones empresas universidades y entidades es cierto que debemos impulsar más la innovación en las pequeñas y medianas empresas

nos corresponde responder a estos retos que representan el futuro de euskadi y simbolizan el bien común lograrlo es una responsabilidad compartida entre las instituciones y la sociedad

el espíritu de nuestro país nuestro modelo es el desarrollo humano sostenible

no hay estado avanzado de bienestar sin una economía fuerte que lo sustente

es la base de nuestro ideario construir una sociedad vasca más justa implica ser más competitivos estamos ejecutando una política económica eficaz

capaz de transformar la riqueza en políticas públicas que garanticen los servicios esenciales modernicen el país y nos permitan invertir en los nuevos sectores económicos de futuro

el primer objetivo de las políticas públicas es garantizar la dignidad de las personas y sus condiciones esenciales de vida la tasa de pobreza en euskadi es la más baja del estado pero hemos asumido el objetivo de reducirla un veinte por ciento esta legislatura

preservando el sistema vasco de protección social nuestro modelo fomenta el crecimiento sostenible y la creación de empleo vamos a primar la competitividad reforzando las actuaciones del plan laui inversión innovación internacionalización

avanzar en un crecimiento sostenible significa lograr más y mejor empleo reducir la tasa de paro por debajo del diez por ciento

hemos aprobado el nuevo plan de industrialización nuestro objetivo es que la industria alcance

la inversión público privada en innovación es clave de desarrollo a futuro y hemos comprometido un crecimiento anual del cinco por ciento del presupuesto público en innovación

nuestro modelo es transparente y se asienta en la colaboración se ha facilitado a la ciudadanía el acceso a los principales proyectos e iniciativas del gobierno a través de irekia

programa de gobierno planificación estratégica programa legislativo nuevo programa marco de reactivación economía y empleo dos mil veinte

este modelo de gestión se alinea con la estrategia dos mil veinte de la unión europea también con la agenda de naciones unidas que compromete los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible clasificados en cinco ámbitos personas prosperidad planeta

hoy diez planes están en vigor y cinco se aprobarán este año convivencia y derechos humanos gobernanza e innovación pública empleo euskera y plan estratégico de turismo comercio y consumo la estrategia se ha contrastado con los agentes implicados en todos los casos

cuentan con actuaciones en desarrollo esto es más del noventa por ciento las iniciativa en marcha son quinientos treinta y nueve sobre seiscientos cincuenta y cinco más del ochenta por ciento

hemos aprobado cuatro puertos y transporte marítimo sostenibilidad energética de la administración pública ley contra el dopaje y patrimonio cultural el objetivo es aprobar este año el proyecto de ley de acceso y ejercicio de las profesiones del deporte y a esto se añade la tramitación propuesta por los grupos que sustentan al gobierno de tres proposiciones de ley

transparencia y participación ciudadana y organización y funcionamiento del sector público además este primer semestre pasado el parlamento ha aprobado las siguientes leyes modificación de la ley cuatro barra dos mil catorce de creación del instituto de la memoria la convivencia y los derechos humanos presupuestos generales de la comunidad

el grado de cumplimiento del programa legislativo del gobierno se encuentra por encima de los objetivos fijados para este primer año

el rigor en la gestión pública el gobierno trabaja con el marco económico y presupuestario dos mil diecisiete dos mil veinte como herramienta para garantizar

el escenario macroeconómico es de crecimiento moderado en la economía mundial con factores de riesgo en europa como pueden ser el impacto negativo del brexit

tipos de interés tipo de cambio o precio del petróleo en euskadi vamos a pasar de incrementos del producto interior bruto en el entorno del tres por ciento

el escenario en nuestro caso está siendo positivo por cuatro razones es un crecimiento alto respecto al entorno

una creación de empleo sostenida entre el uno coma nueve por ciento de este año y el uno coma tres por ciento de dos mil veinte año en el que la tasa de paro se situaría por debajo del diez por ciento

el crecimiento será compatible con un incremento de la productividad cercano al uno por ciento y el modelo de crecimiento será equilibrado

teniendo en cuenta también posibles procesos de desaceleración y estabilización cabe destacar algunos objetivos de programa que tienen reflejo presupuestario compromiso general de mantener las políticas sociales y la calidad de los servicios recuérdese que salud y educación representan el sesenta por ciento del gasto elevar un cinco por ciento anual los gastos de innovación proporcionar una primera experiencia laboral a veinte mil jóvenes

renovación de infraestructuras en educación y sanidad mantenimiento de la renta de garantía de ingresos y derechos subjetivo de vivienda y política de apoyo a las familias

es indudable que el marco económico y presupuestario contempla un incremento del gasto este marco se ve además afectado por el efecto de la consolidación fiscal el déficit se reducirá al cero coma cuatro por ciento el año dos mil dieciocho

en dos mil veinte y además la regla de europea de gasto limita la disponibilidad presupuestaria en términos de inversión en definitiva

rigurosa y ajustada de los recursos públicos va a seguir siendo imprescindible para todo el periodo esta condición necesaria podría no ser suficiente porque la sostenibilidad de las políticas públicas exige garantizar la suficiencia financiera

en el que los gastos de cada ejercicio no podrán superar a los ingresos el marco económico y presupuestario dos mil veinte define el modelo de gestión del gobierno y orienta la necesidad de avanzar desde el acuerdo nuestro modelo de desarrollo humano sostenible es social y económico es transparente y se asienta en la colaboración nuestro modelo prima el acuerdo

estos son los principales hechos del gobierno en diez meses de legislatura

el programa legislativo se está cumpliendo por encima de las previsiones los programas y medidas de apoyo puestos en marcha superan

los acuerdos con el gobierno español en la comisión mixta del concierto y la junta de seguridad han supuesto un reconocimiento de la singularidad de nuestro autogobierno y la bilateralidad

me refiero ahora a nuestras prioridades la respuesta a los retos globales que planteé en el debate de investidura prioridad uno educación

asegurando la equidad y avanzando hacia la excelencia impulsamos políticas que integran la calidad apostamos por la cultura de la evaluación

primamos la formación de la comunidad educadora avanzamos en el plan de mejora con la extensión del plurilingüismo o la educación integral con el euskera como eje central vehicular hemos reforzado nuestro modelo de formación profesional dual en relación con la empresa y lo hemos extendido a la universidad reconozco los problemas hemos avanzado en la equidad tenemos que mejorar en excelencia nuestro reto es obtener unos

dos reto demográfico y apuesta por la juventud hemos aprobado la nueva política de vivienda y el programa de empleo juvenil hemos ampliado el apoyo a la familia y la natalidad los programas de conciliación

o la atención a las personas mayores hemos definido la política de integración de la inmigración trabajando con las diputaciones forales eudel y el tercer sector

procedemos a la renovación y rejuvenecimiento de plantillas en la administración pública reconozco los problemas tenemos mucho que avanzar en todas las medidas contempladas en el plan estratégico de infancia y familia tres innovación

hemos adoptado la estrategia de especialización inteligente ris tres hemos aprobado el plan de industrialización también el programa de atracción de inversiones y de innovación

reconozco los problemas tenemos que avanzar en el apoyo a la economía real especialmente las pequeñas y medianas empresas en el apoyo a la innovación internacionalización

tenemos que trasladar el crecimiento a una mayor generación de empleo de calidad reducir la precariedad laboral muy especialmente entre la juventud mujeres o personas trabajadoras incorporadas tras la reforma laboral prioridad cuatro

impulsamos la promoción de euskadi como atractivo turístico y cultural

actualizando la estrategia euskadi basque country dos mil veinte que presentaremos a principios de año con estas siete prioridades

así como la creación de la primera institución territorial en iparralde visión vasca sobre el futuro de la unión europea documento comprometido en el encuentro de trabajo mantenido con el presidente jean claude juncker

presencia propia de euskadi en setenta y seis países del mundo red de seis socios estratégicos en los territorios de oportunidad futura para euskadi

participación en setenta y cinco redes internacionales red social global network con el objetivo de proyectar euskadi en el mundo reforzando la participación de las euskal etxeak

agenda basque country dos mil treinta de implementación de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible

en euskadi reconozco los problemas ganar dimensión en el exterior exige mayor coordinación

institucionalmente en el consorcio de internacionalización con los agentes económicos empresas universidades centros tecnológicos cámaras de comercio e instituciones públicas

para crecer en el escenario global educación rejuvenecimiento digitalización internacionalización

desde marzo de dos mil trece euskadi crece y crea empleo de forma paulatina son cincuenta y tres meses con dientes de sierra pero en tendencia positiva

mantenemos la previsión de crecimiento para este año en el entorno del tres por ciento

ha aumentado un dos coma dos por ciento la tasa de paro se sitúa en el once por ciento

vamos por el buen camino sí pero no nos conformamos nos corresponde mantener este rumbo garantizar un escenario de estabilidad y certidumbre

tenemos la oportunidad de dar un nuevo impulso a la economía vasca y recuperar todos los empleos perdidos durante la crisis esta es la prioridad del país

eta instituzionalean sortzen duen desitxuraketa comparto una mirada esperanzada en relación a la solidaridad con las víctimas del terrorismo el diez de marzo víspera del día europeo de las víctimas del terrorismo el gobierno vasco convocó una concentración en la que tomaron parte representaciones sociales políticas e institucionales

este acto constituye una manifestación de unidad sin precedentes porque todos los grupos parlamentarios tomaron parte activa en el mismo

la sociedad vasca avanza y esta unidad es motivo de esperanza

el consejo de gobierno lo va a aprobar después de haber recibido diez documentos con aportaciones de los grupos parlamentarios y asociaciones hemos tomado en consideración

planteo una invitación a compartir sus siete retos estratégicos final ordenado de la violencia y el terrorismo el siguiente paso será la disolución

que en lo que esté en nuestra mano vamos a favorecer porque es una exigencia social

clarificación del pasado que sirva para conocer la realidad y el impacto que tuvieron el terrorismo y la violencia políticas públicas de víctimas para que todas

instituto gogora como espacio para compartir las políticas públicas de memoria normalizar y pacificar la política penal penitenciaria y de reinserción

y promoción de una cultura de convivencia solidaridad cooperación y derechos humanos en línea con la agenda dos mil treinta de naciones unidas

el encuentro social para la convivencia que propugnamos planteo aplicar la voluntad de diálogo y el espíritu de acuerdo demostrados en el instituto gogora a la ponencia de memoria y convivencia de este parlamento el diálogo y el acuerdo son la elección estratégica más importante en el ámbito de la convivencia promocionar esta cultura de la convivencia requiere una memoria critica de lo ocurrido y soy consciente de nuestra responsabilidad institucional

en este sentido el día treinta de septiembre participaré junto a la presidenta de navarra uxue barkos

de gurs durante la guerra civil la recuperación del listado de las personas allí recluidas ha sido posible gracias al compromiso demostrado por el gobierno en el exilio del lehendakari aguirre

la democracia y los derechos humanos desde el primer gobierno vasco

un compromiso compartido al que damos hoy continuidad termino este apartado haciendo referencia al terrorismo internacional de pretexto religioso

la preocupación por esta amenaza el mes de junio plantee la creación de un grupo de trabajo con la participación de los departamentos de seguridad

y la secretaria general de derechos humanos convivencia y cooperación nuestro planteamiento parte de algunas premisas que configuran el diagnóstico

reconocer la enorme complejidad de la amenaza aceptar que no existe una estrategia infalible y asumir

la necesidad de una unidad de coordinación europea de los servicios de inteligencia y seguridad policial no todo está en nuestra mano pero sí debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano el gobierno vasco trabaja para responder a esta amenaza desde cuatro ámbitos

respuesta policial integración intercultural e interreligiosa en la sociedad

a los esfuerzos internacionales el documento marco que estamos elaborando y que presentaremos en este parlamento desarrollará un plan de actuación en torno a estos cuatro ejes

es necesario elevar a la máxima categoría de valor compartido el legado de la capitalidad cultural convivir es vivir con hoy

auspiciado por la asamblea general de las naciones unidas el lema de este año es juntos por la paz respeto seguridad y dignidad para todos

en este día y cito en tiempos de inseguridad las comunidades de apariencia diferente se convierten en chivos expiatorios

debemos resistir frente al cinismo que divide a las comunidades y nos presenta a nuestros vecinos como los otros juntos hagamos frente a la intolerancia y defendamos los derechos humanos construyamos puentes

hasta aquí la cita este es el reto estratégico de la convivencia para la sociedad vasca y europea en los próximos tiempos

la visión de futuro del autogobierno vasco esta cuestión está siendo compartida por todos los grupos en la ponencia de autogobierno

estructuro mi intervención tomando como referencia los compromisos asumidos en nuestro programa de gobierno

hemos aprobado un informe actualizado sobre las competencias no transferidas

completado en mil novecientos noventa y cinco y dos mil uno con el informe de prioridades

por este parlamento este informe se presenta en cuatro bloques primero transferencias efectuadas entre los años

en concreto se han producido treinta y cinco traspasos estos dieciocho años los más relevantes relacionados con administración de justicia autopistas

cinco transferencias que se encontraban catalogadas como pendientes

por motivo de cambios en la realidad jurídico económica o la afección de las políticas de la unión europea tercero seis nuevas propuestas

listado actualizado de las transferencias pendientes con treinta y uno materias

se trata de alumbrar una posición favorecedora para lograr los treinta y siete traspasos pendientes que deberán ser negociados y acordados en la comisión mixta de transferencias

nuestro gobierno ha declarado y demostrado voluntad de negociación y acuerdo

la vía de la bilateralidad reactivada en la comisión mixta del concierto y la junta de seguridad es el camino que nos puede permitir zanjar el contencioso estatutario

de incumplimiento el segundo compromiso del programa de gobierno es la consecución de un nuevo marco jurídico político para euskadi

nuestro gobierno va a mantener la actitud de facilitar el avance en el trabajo de la ponencia más en concreto expresamos nuestra disposición a que como décimos textualmente se acuerde con el mayor consenso una formulación abierta pero concreta de bases y principios para la reforma y actualización del autogobierno

este documento de bases y principios debería servir como punto de partida para la elaboración del texto articulado de una nueva propuesta política de futuro para euskadi

de que el ideal del autogobierno se encuentra en la concordia y la convivencia entre identidades diferentes sobre la base del respeto y reconocimiento mutuo

sobre la base del respeto y reconocimiento mutuo desde la puesta en marcha de la ponencia se me ha reclamado en sede parlamentaria y en diferentes ocasiones

al futuro del autogobierno he sido siempre propositivo y al mismo tiempo respetuoso con los trabajos de la ponencia

soy consciente de que el autogobierno es nuestro bien común nos une su aportación al bienestar crecimiento económico justicia social y equidad

lograr mayor calidad de vida para una sociedad que queremos responsable y protagonista de su futuro hoy con el objetivo de contribuir a favorecer el máximo consenso

como lehendakari cinco reflexiones dirigidas a la representación parlamentaria en aras a facilitar el desarrollo y avance de sus trabajos

ubicar la cuestión del autogobierno vasco en el ámbito político de la unión europea analizar el reconocimiento de euskadi como nación y la consideración de los derechos históricos

asentar el concepto de bilateralidad y su aplicación efectiva y disponer de una precisa capacidad de decisión en el ámbito del estado

y la acción internacional reiterando mi voluntad de contribuir a los trabajos de la ponencia expongo mi primera reflexión

desde su fundación el proyecto político para construir una federación de naciones y pueblos en torno a un proyecto compartido hoy

ciudades y naciones sin estado constituye una tendencia general es necesario que el protagonismo político y decisorio se transfiera a los pueblos y naciones que integran la diversidad europea es clave para vertebrar el proyecto europeo y conectarlo con la ciudadanía

en este nuevo escenario sería necesario configurar una estructura basada en el principio de subsidiariedad que permita un reparto de competencias y también de soberanía

avanzar en un modelo capaz de unir los elementos positivos de los modelos confederal y federal que limite la exclusividad del estado nación

también una alternativa constructiva para la ineludible reforma del modelo de estado que debe partir de la asunción de su propia realidad plurinacional

en este sentido es importante recordar que en nuestro programa de gobierno contempla que el modelo autonómico vigente en el estado español precisa de una reformulación

segunda reflexión reconocimiento de euskadi como nación y consideración de los derechos históricos como poder constituyente

tanto desde una perspectiva histórica política e institucional como también cultural euskadi es una nación política en un estado descentralizado

el estado tiene la obligación y la necesidad de buscar una solución política a las aspiraciones nacionales legítimas de euskadi y cataluña no hay otro camino

reconocida expresamente en la disposición adicional primera de la constitución que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales

es el caso de navarra y de araba gipuzkoa y bizkaia

a esta legitimidad hay que añadir la disposición adicional única del estatuto de gernika

ha establecido la importancia y alcance de los derechos históricos esta legitimidad trae consigo dos consecuencias en los principios euskadi constituye de forma indubitada una realidad nacional propia en el ámbito del poder político

que se establezca y garantice sus poderes y competencias somos nación y seguimos en proceso de construcción nacional

esto es la voluntad de un proyecto político diferenciado que no coincide plenamente con el que se plantea por determinados ámbitos de representación del estado

los derechos históricos son uno de los elementos que han contribuido a configurar el sentido de nación vasca son hecho singular y elemento legitimador de nuestro poder constituyente

el nuevo estatus seria la expresión jurídico política de una identidad nacional histórica con voluntad de pervivir expresión institucional actualizada de una identidad colectiva

y en mil novecientos setenta y nueve y que ahora reitera su vocación de renovarse también como punto de encuentro de la sociedad con su constitutiva pluralidad

partimos del reconocimiento de la singularidad de euskadi con dos referencias

que demanda una lectura actualizadora basada en una confianza recíproca

no implica renuncia del pueblo vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca

sigo abogando por la institucionalización del derecho de la ciudadanía a ser consultada sobre su futuro de manera legal y pactada conjugando el principio democrático y el de legalidad considero que es necesario habilitar cauces legales

que mediante decisión expresa y clara de sus instituciones parlamentarias de autogobierno quieran consultar a la ciudadanía sobre su futuro puedan hacerlo con plenas garantías

el gran reto actual es conseguir un consenso plural y solido en torno a un gran proyecto de autogobierno planteo la posibilidad de acordar un nuevo pacto político expresión de nuestra nacionalidad propia y diferenciada tal y como recoger el artículo primero

mejores instrumentos para desarrollar nuestra personalidad y responder de forma eficaz a los retos globales del país entre los que destaco una economía social con rostro humano el nuevo marco debería abocar a una renovación y fortalecimiento de la naturaleza pactada en nuestras instituciones políticas

no quede al arbitrio de una de las partes laugarren hausnarketa aldebikotasuna eta haren aplikazio bermatzailea sendotzea

hasta aquí las cinco reflexiones que comparto para contribuir a avanzar en el objetivo de consensuar unas bases y principios para la reforma y actualización del autogobierno

la vía vasca toma como base el elemento legitimador de los derechos históricos

para seguir avanzando en la construcción nacional y social de euskadi este objetivo se puede alcanzar con un acuerdo pacto

competencias poder hacer suficiencia financiera recursos para hacer y bilateralidad no interferir

planteo la reflexión sobre un nuevo estatus de autogobierno que reconozca la singularidad de la nación vasca y extienda la experiencia de concertación fiscal y financiera a la relación política

concierto económico y concierto político son dos pilares que permiten llenar del máximo contenido y al mayor nivel los poderes efectivos de euskadi con todas las garantías

considero necesario avanzar en el reconocimiento jurídico político y también social y cultural de las realidades nacionales vasca catalana y gallega además de la española

en el respeto de los diversos pueblos y culturas que la integran una europa de gobernanza multinivel más social y también más democrática

avanzar en una decisión política aconseja asumir

afrontar con una visión constructiva la redistribución de la soberanía del estado y favorecer la defensa de la identidad de sus respectivos pueblos la salida del laberinto político territorial se encuentra en el horizonte del estado confederado

estabilidad y consenso en el inicio de este curso político tenemos la oportunidad de conjugar estos valores en relación a cinco cuestiones fundamentales

estamos elaborando el anteproyecto con tres referencias directrices económico presupuestarias

del consejo de finanzas y nueva política fiscal en este sentido hemos aportado la evaluación de la reforma fiscal corresponde a los partidos abrir una negociación política para que las juntas generales aprueben las nuevas medidas nuestra posición es mantener un equilibrio en el doble objetivo de garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas

aprobar el presupuesto requiere más apoyos que los propios de los partidos que respaldan al gobierno nuestra disposición es abierta al dialogo y la negociación con todos los grupos dos reforma de la renta de garantía de ingresos y sistema vasco de protección social

este ha sido el instrumento que ha demostrado la solidaridad de la ciudadanía vasca y ha fortalecido nuestra cohesión el gobierno ha presentado en este parlamento veinte medidas para mejorar la gestión y garantizar la sostenibilidad de la renta de garantía de ingresos

impulsar el fin último de la ayuda esto es facilitar la empleabilidad de las personas en edad laboral nos corresponde aplicar

para dotar de mayor nivel de control y eficiencia al sistema nos corresponde fortalecer el consenso institucional y político para preservar en su conjunto

tres formación hemos abierto un proceso participativo para alcanzar un acuerdo por la educación con el objetivo de reforzar la estabilidad y calidad de la educación

tanto en la formación profesional como en la universidad vamos a impulsar el sistema universitario sobre los principios de autoexigencia eficacia y corresponsabilidad

trabajamos en colaboración con el tejido empresarial para facilitar una primera experiencia laboral a veinte mil jóvenes

y sociales cuarto plan de convivencia y derechos humanos dos mil veinte vamos a abrir una nueva etapa

vamos a primar las políticas públicas de atención y reconocimiento a las víctimas nos proponemos normalizar la política penitenciaria

nuestra propuesta es extender a la relación entre todos los grupos

en el encuentro social para la convivencia cinco avanzar en el cumplimiento íntegro del estatuto y actualizar el autogobierno

precisamos del respaldo parlamentario político y social

apelo también a primar el consenso en la elaboración de las bases y principios para la reforma y actualización del autogobierno el acuerdo interno

y el reconocimiento de la realidad plurinacional del estado configuran el escenario en el que demostrar capacidad política para pactar un nuevo estatus de autogobierno